por un lado a los portavoces que llevan esta materia de los grupos que apoyan al gobierno creo que

en un texto concreto supone un paso importante en relación a lo que puede ser abrir una vía de estudio en relación a ampliar las

a la conciliación para la contratación de personas cuidadoras que cuiden a los menores y también que se puedan estudiar otras fórmulas porque como también

no se trata solo de arbitrar una medida concreta sino que cuando hablamos de ayudas a las familias de ayudas a la conciliación ayudas específicamente a las familias en un momento en que lo están pasando mal yo creo que hay que ser sensibles hay que se receptivos y yo desde luego quiero agradecer hoy el haber visto esa

en el ejecutivo y plasmada concretamente en el texto que vamos a sacar entre todos los grupos con representación en esta cámara

y que se estudiara la posibilidad y que más que estudiar se ampliara con carácter inmediato todas las ayudas destinadas a la conciliación y especialmente las destinadas a las familias vascas pero tengo que decir que mi iniciativa estaba

que el gobierno recientemente aprobó una orden concreta y sí que

por eh bildu pues también tuvimos oportunidad de ajustar también el contenido de las propuestas

orden nos parecía importante que se pueda modificar el pago de las ayudas previstas en la orden de forma que estas se puedan abonar

también nos parecía importante que se puedan incrementar las cuantías del sistema de renta estandarizada fijadas en la orden

si es mayor de veinte mil euros el setenta y cinco por ciento y si es menor

un cien por ciento creíamos que ese umbral era oportuno ampliarlo

que las ayudas previstas para el curso escolar dos mil veinte dos mil veintiuno

hasta después del verano visto también

y que en verano no pudiera haber colonias o este tipo de actividades y por lo tanto que las familias tuvieran una necesidad también de contratar pues a una persona cuidadora para sus hijos creo que también como decía antes

si fuesen necesario si se extendiera la situación de la pandemia y finalmente me voy a referir brevemente al punto sobre el que hay un acuerdo que me parece que es algo importante y como decía

gainera aho batez aterako delako que es que el parlamento vasco

con el fin de facilitar el modo de pago la tramitación y los requisitos de las ayudas previstas y las que puedan venir en un futuro de manera que una vez que se acepte la solicitud se materialice un modo de pago más flexible

ateratzea por lo tanto bueno satisfacción siempre nos hubiera gustado que se hubiera podido llegar a un acuerdo más amplio pero sin duda yo creo que el esfuerzo

denboragatik barkamena eskatu behar da bueno hoy debatimos de nuevo

cuando empezábamos a ver el tema de las ayudas

así lo avisamos en el pleno de control de hace unas semanas

podríamos definir las ayudas como que estas ayudas son parches y tiritas

curan por sí solas pues no y proporcionan alivio pues sí van a la raíz de la enfermedad no son iguales y accesibles para todas pues no pues un poco lo que pasa con estas ayudas

los equilibrios y los sobresfuerzos que se están pidiendo en los hogares con los confinamientos el teletrabajo y por otro lado la desigualdad socioeconómica y laboral de las mujeres

la estructura de posición respecto a las políticas de conciliación y de corresponsabilidad siempre salimos perdiendo las soluciones a esta situación tienen que estar muy bien medidas y trabajadas el cuidado tiene que ser un derecho y no un privilegio

en el pleno de control y sobre todo tienen que nacer estas ayudas de una evaluación del impacto de género para que las políticas de cuidados

no contribuyan a más precariedad estamos viendo aprobadas unas órdenes

a algunas mujeres y a algunas familias que deberían tener acceso a las mismas y me gustaría poner

a los que no les van a llegar yo estoy muy contenta también del esfuerzo que hemos hecho me parece que es un ejercicio de pedagogía democrática lo que hemos vivido de esa sala creo que

es bueno para todas aunque siempre se pierden cosas en el camino y eso también que somos conscientes yo me gustaría ahora en este momento que tengo este altavoz poder hablar de tres

a los que no les van a llegar aunque lleguemos a este acuerdo estamos hablando de las familias monomarentales a las que por supuesto debería llegarles la ayuda pero hay una pequeña trampa

en el decreto tienen que ser familias monomarentales o monoparentales que no estén en régimen de custodia compartida estamos ya debatiendo la ley de relaciones familiares y todas las expertas nos están avisando de que la custodia compartida

es una trampa también no ante la violencia machista y como dice

excelente monólogo que la violencia se expresa de muchas formas y

otro colectivo las familias en mayor situación de vulnerabilidad que el decreto solo prevé que

y otra vez nos volvemos a encontrar que el padrón es la llave de acceso y el reconocimiento a derechos y hasta el ararteko tiene recomendaciones específicas sobre esto y bueno y que ha traído problemas también a las personas solicitantes de rgi

un acuerdo de la legislatura anterior y no se entiende que no se recojan más supuestos para acreditar la residencia por ejemplo

a quien lo tiene más difícil a personas migrantes a mujeres migradas a personas en riesgo de exclusión social a cualquier persona que esté viviendo hoy de alquiler en un piso donde no se le permite empadronarse y por último

en el mercado laboral esto no es nuevo las tasas de empleabilidad de las mujeres

la precariedad en la temporalidad nos afecta y por tanto

requisito discrimina justo a las mujeres que están en situación económica más vulnerable y es curioso porque

que lo reconocía y que decía que había que abordarlo y bueno pues no se ha hecho

y nosotras en nuestra enmienda así lo recogíamos veíamos lo primero que toda política debían nacer de una evaluación previa del impacto de género y veíamos que estas ayudas

esa evaluación luego lo segundo que vemos pues que las necesidades sociales de la ciudadanía no son privilegios es que son derechos y en un estado del bienestar decente se deberían garantizar estos derechos y no solo atender a los casos más graves

cubriendo con las mismas garantías que se cubre el derecho a la educación o a la salud y no se valoran igual por último

y contribuyendo a la cadena global de cuidados antes que dar una respuesta contundente desde lo público o comunitario y

nuestra enmienda también recogía además la necesidad de mantener el plan me cuida

un poco pensar para cuándo una reflexión no a plazo largo y

hacia un modelo de cuidados público o comunitario para cuándo vamos a reconocer el valor estratégico y político

por qué estamos atrapadas en los cuidados porque en este pleno salen una y otra vez y es necesario transitar hacia ahí necesitamos un sistema público de cuidados lo necesitamos lo estamos viendo

cada día cada pleno en cada pleno ordinario y en cada pleno de control

en red en comunidad incluso con un plan de empleo garantizado que blinde las condiciones laborales de las personas que cuidan

cuidados y no más parches ni tiritas este decreto

y seguimos sin hablar del debate real que la pregunta no es quién cuida como dice la campaña

la pregunta es cuándo y cómo van a asumir las instituciones que es su deber cuidar también bueno

por corresponsabilidad por responsabilidad en la enmienda transaccional que hemos acordado hay mejoras que tratan de ampliar el alcance de ese decreto ya está en vigor

pues va a ser bueno para todas y que estamos en vísperas del

que reivindica tejer redes feministas contra el machismo contra el racismo

políticas de conciliación efectivas un sistema público o comunitario de cuidados que asegure calidad universalidad

hoy mismo vuelve a estar convocada una huelga por los cuidados y por eso vamos a votar a favor de la enmienda transaccional

porque siempre yo creo que además mi grupo parlamentario siempre está trabajando en este sentido no pero no por ello vamos a renunciar a que el cuidado sea un derecho y lo sea cuanto antes eskerrik asko

hoy debatimos sobre ayudas a conciliación de la vida familiar y laboral en concreto en el pleno del diecinueve de febrero del dos mil veintiuno la consejera de igualdad justicia y políticas sociales la señora artolazabal

que da origen al debate de hoy en este pleno así como también contestó una pregunta de elkarrekin podemos sobre

orden de ayudas a la contratación para el cuidado de menores también teníamos en el punto sexto del pleno de hoy una proposición no de ley planteada ya en noviembre del dos mil veinte por el grupo popular

se ha solicitado que se debata conjuntamente con este punto segundo

jurídicamente por acuerdo de la mesa tengamos que votar por un lado la enmienda transaccional y las enmiendas del punto sexto que siguen vivas al no haberse retirado ese punto y tenemos que tener en cuenta que

fue remitida para su publicación en el boletín oficial el ocho de febrero del dos mil veintiuno es decir ya estaba remitida antes de que

por parte de la consejera de igualdad justicia y políticas sociales la iniciativa parte de la afirmación de que

y se está poniendo en duda el valor de las medidas adoptadas antes y durante

de las ayudas a la conciliación y por otro lado en la iniciativa del partido popular se hacía referencia a la necesidad de la aprobación cuanto antes

de la nueva orden de ayudas para la contratación para cuidados de menores y esa publicación

aprobada en estos momentos pero mi grupo parlamentario considera que desde luego no podemos poner en duda que se han venido llevando a cabo medidas

de ayudas en la contratación durante los últimos años y también durante la pandemia en la intervención en el pleno del diecinueve de febrero de la consejera manifestó que muchas de las ayudas y modificaciones adoptadas

dentro del presupuesto de la comunidad autónoma vasca cuarenta y uno millónes de euros a ayudas a la conciliación es decir el doce por ciento del presupuesto del departamento

de euros para apoyar a las familias vascas en total a todo tipo de familias y además añade un esfuerzo para llegar a familias más

se ha procedido a analizar constantemente el resultado e impacto de la inversión en las familias para proponer mejoras en las mismas y se ha introducido

para la contratación de personas trabajadoras cuidadoras de hijos e hijas durante el curso escolar dos mil veinte

de cuatro millónes de euros con estas ayudas se cumplen tres objetivos ayudar a las familias reconocer el trabajo doméstico y las tareas

cuidados fomentando la contratación legal de esas personas trabajadoras y ayudar fundamentalmente a que las mujeres no tengan que tener que elegir entre su vida laboral o su profesión y tener que conciliar con las necesidades del cuidado en sus familias

de la pandemia incluso antes de que se hiciera la declaración del estado de alarma porque se procedió a reforzar y flexibilizar esas ayudas incrementando recursos destinados a ellas y aparte incluso además duplicando las cuantías entre las medidas de flexibilidad

de limitar el periodo mínimo subvencionable de cincuenta y nueve días

y además también se incrementaban las cuantías en el caso de ayudas a familias numerosas a familias que cuentan con un miembro en situación de dependencia y cuidan de ella

y se acaba como he dicho de publicar la nueva línea de ayudas a la contratación de personas cuidadoras habiendo arrancado ya para solicitar las ayudas que se pueden pedir desde este lunes uno de marzo y se pueden solicitar además con carácter retroactivo todas desde el uno de septiembre

de este curso escolar con estas ayudas se puede proceder a cubrir el setenta por ciento al cien por ciento del costo de la cotización a la seguridad social del trabajador o trabajadora contratada para el cuidado de hijos no solo hasta los tres años sino que se ha hecho un esfuerzo importante llegando a hasta los catorce años y vamos a seguir trabajando para garantizar una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los cuidados de nuestras familias lo que hará que sigamos avanzando en la igualdad

esa reorganización y revisión del modelo de cuidados que es un compromiso asumido ya dentro del acuerdo de gobierno los ciudadanos fundamentalmente las mujeres han tenido que conciliar durante la pandemia en condiciones muy diferentes a lo normal con colegios cerrados con un confinamiento en casa largo

al paro y han tenido que pasar un tiempo

a lo que estaban estábamos acostumbrados hasta este momento y que ha sido originado por la incidencia de la pandemia pero se ha trabajado por facilitar durante todo este periodo esa conciliación

gustado que esta orden hubiera salido antes pero evidentemente

no es sencilla ya está encima de la mesa y todas las familias pueden solicitarlo desde

del curso escolar también se puso de manifiesto el deseo y el interés de la consejera de seguir estudiando y mejorando para que se puedan introducir

ayudas a la conciliación yo creo que en esta nosotros se ha llegado a una enmienda transaccional el grupo nacionalista el grupo socialista no estábamos de acuerdo en la totalidad de la enmienda

respecto al primer punto como he puesto de manifiesto dentro de mi intervención creo que puesto de manifiesto que se han hecho muchos esfuerzos se han hecho muchas cosas en los últimos años y también

también estamos de acuerdo en que se realice una reflexión con el fin de mejorar

de pago y estudiar la forma más adecuada para poder adelantar

de las ayudas a la conciliación se estudiará la forma mejor de hacerlo para que evidentemente también se garantice una seguridad jurídica que evite también

una complejidad de la gestión importante que ustedes saben que esto se puede evidentemente producir entonces hay que hacer un estudio para conseguir

pero también no perder esa seguridad jurídica

tenemos y no dificultar

de todas estas ayudas que pudiera producir también un retraso dentro de las mismas yo creo que el acuerdo que al que hemos llegado es

nosotros vamos a votar el punto dos de la enmienda transaccional no vamos a votar a favor del punto

porque no estábamos de acuerdo con ese punto uno pero también tenemos que votar luego al no haberse retirado el punto sexto las enmiendas que quedan vivas y que por tanto dentro de ese en ese punto nosotros votaremos a favor de nuestra enmienda la enmienda presentada

pero que tampoco tiene mayor trascendencia porque lo que se recogía

en noviembre del dos mil veinte cuando presentamos esta enmienda a la totalidad

porque dentro de esa enmienda se decía hacer el esfuerzo de ampliar de tres a catorce años ese esfuerzo se ha hecho y está recogido en la orden que ha sido aprobada ya

del empeño de este gobierno para ayudar a las familias es verdad que los cuidados en general bien sean a personas mayores personas con dependencia o a niños y niñas

la consejera artolazabal para que todas las personas gocen de derecho a cuidar y ser cuidadas y que este derecho se ejerza atendiendo criterios de justicia social y de género la transversalidad es una herramienta que se aplica para poder impulsar como también dijo la sailburu una reorganización social de los cuidados que entre otros objetivos permita un reparto equilibrado de los mismos

izango eliminación de la limitación del período mínimo subvencionable setenta millónes de euros para las familias cuarenta y uno millónes de euros para la conciliación

ante nuevas o distintas necesidades jartzen dena egiten dena

eskatzea lehen esan dudan bezala ulertzen dugu eta gainera beharrezkoa da las ayudas para contratar cuidadores para hijos e hijas entre cero a catorce años han mejorado en base a la situación y en base a las nuevas necesidades mejora continua y adaptación la señora artolazabal explicó que el análisis y la adecuación de estas

se comparte y contrasta con las asociaciones laguntzak dekretu berriarekin zero hamalau urtera doaz gizonezkoek lanorduan murrizketak

gracias señora presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios

en cambiar en hacer que el invierno demográfico llegue a su fin el veintidós coma dos por ciento de nuestra población tiene más de sesenta y cinco años

envejecidos pero lo grave no es esto lo grave es que cada año nacen menos niños en dos mil veinte en concreto

de seguir así nos dirigimos irremediablemente hacia la extinción una región vieja es por definición decadente y no podemos mirar hacia otro lado con este problema nuestro compromiso como políticos es dejar en herencia a nuestros hijos un sistema sostenible y sostenibilidad supone no solo cuestiones ecológicas sino juventud estructura y futuro y francamente con la tendencia actual ese no parece ser nuestro horizonte tenemos por tanto un compromiso con las familias con todo tipo de familias pues son las que pueden cambiar la situación y en consecuencia debemos facilitar la conciliación

en dar facilidades para tener hijos y esto es fundamental

vemos cómo la ideología y el sectarismo se inmiscuye

en vox creemos que lo que se necesita es coger el toro por los cuernos facilitar que las ayudas lleguen lo más rápido posible

los recursos hagan por ejemplo una comparación entre el despilfarro económico que supone todo el fin político que tenemos aquí y las ayudas que se están dando

notable lo que tenemos muy claro es que es necesario menos políticos y más niños eso es lo que nos hace falta todo lo que vaya por este camino desde luego contará por nuestra ayuda muchas gracias

bueno el objetivo de la iniciativa del partido popular era en un momento delicado para las familias

fuera sensible a esta situación instar al gobierno vasco a modificar

criterios establecidos en las órdenes ya vigentes de apoyo a la contratación de personas cuidadoras para los menores y creo que hoy

un paso para que obviamente el gobierno pueda ser sensible a esta situación y

las cuantías de estas ayudas y sobre todo lo que tiene que ver con adelantar el pago de estas ayudas que sin duda es lo que necesitan las familias ayudas como decía

en que hay familias que lo están pasando mal que hay necesidad de contratar a personas que cuiden a los hijos sobre todo en un momento también de incertidumbre

en un momento en el que tampoco sabemos qué va a pasar en verano con las colonias que además

pasan los niños los veranos y por lo tanto creo que es oportuno que se abra esa

por parte del gobierno vasco y se vaya más allá de las medidas que actualmente están previstas besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

zurea da hitza sí presidenta desde luego por nuestra parte agradecer el esfuerzo

intervención que nosotros creemos que es importante

esa reflexión de hecho es que ya he dicho también en mi intervención que esa reflexión se está realizando y se ha venido efectuando modificaciones para irse adaptando al momento evidentemente la pandemia ha tenido situaciones muy diferentes en pleno confinamiento con todas las personas obligadas a estar y todos los ciudadanos a estar en nuestras casas las necesidades de conciliación

porque se reducían porque tenías la obligación de estar en casa ha habido más complejidad en otros momentos ha habido situaciones muy distintas se han ido adaptando se hizo rápidamente se ha hecho un esfuerzo importante señora gonzález para nosotros

hombre pasar hacer el esfuerzo de cuarenta millónes de euros en conciliación setenta millónes de apoyo a las familias pasar de

en las ayudas a la contratación pasar de tres a catorce años con el esfuerzo que lleva eso y

evidentemente no estamos hablando de eso y se va a seguir reflexionando para seguir mejorando y adaptándose a esta situación tan excepcional que todos los ciudadanos están viviendo y para conseguir que desde luego llegue al máximo

a las familias que tenían a personas con discapacidad para las víctimas de violencia de género incrementando las cuantías duplicando las cuantías entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo eso se ha hecho y se va a seguir reflexionando y se va a seguir mejorando por eso creo

porque estábamos de acuerdo en ello y por eso vamos a votar a favor del mismo y como he dicho al no

el punto sexto habrá que votar también las enmiendas que siguen vivas al no haberse aprobado por la mesa del parlamento la acumulación de los dos puntos y nosotros votaremos a favor de nuestra enmienda a la totalidad la enmienda presentada por el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista aunque evidentemente no tiene una mayor incidencia porque lo que se recogía dentro de la misma como he dicho era pasarlo de tres a catorce años eso ya está cumplido en la orden que se acaba de aprobar pero bueno para que no se quede ahí

lortu dugu konfiantza ere bai eduki behar da eta yo lo dejo como se suele decir ahí lo dejo que

tik tok youtubers instagram whatsapp influencers

de relaciones digitales que en muchas ocasiones se escapan a nuestros dedos a nuestros ojos y a nuestros oídos

otras extremecen por la carga de violencia que acarrean para las personas más jóvenes por ejemplo mis hijas adolescentes son palabras habituales pero para otras como yo donde ya hay una brecha digital considerable pues no lo son tanto

muy potentes el acoso escolar y el ciberacoso y tenemos el reto de abordarlos desde la perspectiva de los derechos de la infancia y no desde el temor a un entorno que evoluciona más rápido de lo que nos gustaría

sino de prestar acompañamiento y apoyo para que nuestros hijos nuestras hijas nuestras adolescentes puedan ejercer sus derechos

y en qué forma quieren relacionarse a través de la tecnología hoy queremos que el centro del debate político de esta cámara gire en torno a la protección de la infancia contra la violencia frente al acoso escolar y el ciberacoso hoy

lo vamos a llamar acuerdo ciberacoso porque en torno a él hemos conseguido

la infancia que ha sido la gran olvidada de la pandemia porque hemos tomado muchas decisiones desde un punto de vista adultocéntrico no puede ser ahora la gran olvidada

que sean posteriores y hoy es el momento de mirar el impacto que esta situación está teniendo sobre ellas y cómo le damos una respuesta desde la sensibilidad política gure ustez elkarrekin podemos

modu integralean landu ahal izateko porque esto no es un tema del que digamos estos son los datos y suyas son las conclusiones tenemos que abordarlo sobre todo desde la educación sexual desde la educación en valores desde la coeducación porque la violencia no es ajena a las estructuras sociales a los roles de género

a lugar en el mundo que ocupamos y no es ajena a la desigualdad y menos

si pudiesemos les daríamos el icono de me asombra al menos un veinte por ciento del alumnado de primaria y un dieciséis por ciento del alumno de secundaria reconoce haber sufrido acoso o ciberacoso estos son datos del instituto vasco de evaluación

los estudios señalan un claro sesgo de género en cómo está afectando el ciberacoso cuando se cruza con formas de violencia que afectan a mujeres niñas y adolescentes

seis de cada diez familias reconocen que el covid ha provocado que sus hijas

la exposición a pantallas de menores ha aumentado un doscientos por ciento desde el confinamiento

desde el confinamiento ha aumentado un setenta por ciento estos datos están sacados de un estudio sobre ciberseguridad y convivencia que ha hecho la empresa gaptain y que lo ha realizado entre alumnado de nueve y catorce años de centros escolares de bizkaia estamos

que radiquen la desigualdad y aborden las violencias en todas sus formas las propuestas que traemos hoy aquí para la infancia para la adolescencia

desde la perspectiva de la educación y no solamente desde un enfoque punitivo o judicial es por ello que se las resumo brevemente

por un lado la recogida sistematizada de datos y esto es que hay que abordar hay que abordar la carencia de datos sobre acoso escolar y ciberacoso de datos reales

así lo están indicando en todos sus estudios y ante diferentes tipos de violencia tenemos que

desde el acompañamiento y desde la evaluación de estos datos la segunda es partidas presupuestarias suficientes

bien para desarrollar mecanismos de denuncia efectivos adaptados a la infancia y a la adolescencia

las profesionales de la administración pública porque con personas formadas vamos a garantizar una mayor capacidad de detección de casos además

porque creemos desde elkarrekin podemos izquierda unida en la importancia de la educación para cambiar el mundo para construir una ciudadanía de un mundo más igualitario y porque creemos en una escuela pública con recursos suficientes

por último el desarrollar programas para un uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación incorporando al currículum educativo los valores

y ciberconducta tenemos que ser capaces de acompañar a la infancia y la adolescencia en el ejercicio de sus derechos y a sus familias también

legebiltzarkideok es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad unir esfuerzos

también sean sanas e igualitarias y en ese unir esfuerzos

todavía y quiero agradecerles a todas por su apoyo a nuestra propuesta porque yo creo que entendemos

y reconocer a las organizaciones que hacéis incidencia política con vuestras investigaciones que con vuestros datos sustentáis las proposiciones que aquí traemos

pero también queremos agradecer al observatorio a ikusmira

eskerrik asko desde elkarrekin podemos izquierda unida consideramos necesario avanzar en medidas de protección de los derechos de los niños las niñas

consideramos urgente el desarrollo de programas de educación en ciudadanía digital de prevención

y consideramos también que desde las políticas públicas debemos garantizar

brecha estructural alguna ni social que coloque a la infancia y a la adolescencia en una posición de mayor vulnerabilidad y ahora

buenos días señoras y señores parlamentarios me cuesta mucho

entendemos que además nace con muy buena intención y que busca mejorar la vida de nuestros jóvenes y dar cobertura a un tema que a todos nos preocupa

hay más denuncias pero todos sabemos que eso solamente es la punta del iceberg estamos ante un problema silencioso difícil de combatir y que no tiene un origen concreto el acoso puede nacer por cuestiones físicas las críticas al aspecto por cuestiones de origen el racismo pero incluso por la propia ideología algo todo esto intolerable y que por desgracia cada día se repite con más frecuencia

cómo atajar un fenómeno poliédrico que con la aparición de las redes sociales se ha vuelto aún más letal en su versión de ciberacoso los datos están ahí

y es la tercera causa de muerte en este sector de la población la conclusión es clara

por tanto aplaudimos que intenten dar cobertura a este problema y que por fin hablen de cuestiones que importan y que son valiosas para la sociedad

sin embargo nuestro modelo es necesariamente nacional no vemos justo que para esto haya distintos protocolos aquí en cantabria y en la rioja

a que propongan un proyecto de ley en el congreso de los diputados que regule de forma específica escolar y el ciberacoso necesitamos un protocolo de actuación a nivel nacional común por muchos motivos entre otros por agilidad por equidad por solidaridad y por eficacia lo que pedimos es sensatez y menos ideología a la hora de buscar soluciones ante un problema tan grave

la vida de niños y jóvenes quiero además felicitar a la señora gonzález por matizar que hace falta un abordaje integral para luchar contra todas las formas de violencia en eso estamos totalmente

desde vox creemos especialmente relevante fomentar la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa de cara a que desde el anonimato

agradecer a la señora gonzález esta iniciativa creo que son de estas cosas que nos impactan muchísimo en la vida diaria que nos toca

de estas cosas que afectan tanto a los ciudadanos y ciudadanas vascas como es el tema del acoso escolar el acoso escolar que es cualquier forma de maltrato psicológico

como ahora sobre todo en las redes sociales en esto que se viene a llamar ciberacoso estadísticamente el tipo de violencia dominante es el emocional

en la clase y en los patios escolares los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada a la adolescencia

afecta a todo el colectivo humano y al organismo

y sobrepasado por las circunstancias algo que es tremendo

un tipo de violencia escolar que se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por

el sujeto maltratado sea niño o niña queda así expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador generándose como consecuencia de una serie de secuelas psicológicas es muy común por desgracia que el acosado o acosada viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela

puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso por desgracia llega a su materialización hemos tenido aquí en euskadi casos de estos consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad

aquellos niños que tienen diversidad funcional son doblemente victimizados existen muchas modalidades por desgracia de acoso escolar el bloqueo social el hostigamiento la manipulación las coacciones la exclusión social la intimidación las agresiones de todo tipo las amenazas y ahora

existen diversos métodos de prevención y se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales familiares

es la única vía posible de prevención del acoso escolar y la prevención se puede realizar en distintos niveles la prevención primaria es la responsabilidad de los padres de la sociedad en su conjunto y también de los medios de comunicación

dentro de la institución se considera prevención primaria a todas las acciones que contribuyen a mejorar la convivencia y el clima del centro como el empleo de la mediación y el uso de un código de disciplina positiva para la resolución de conflictos hay medidas que ya se han puesto en marcha

diversos instrumentos para prevenir y gestionar esta situación entre ellos podemos destacar la guía de actuación en los centros educativos de la comunidad autónoma ante el acoso escolar

que contiene orientaciones para la actuación en los centros educativos ante un acoso de ciberacoso

que es un espacio dirigido a niños y niñas adolescentes con un teléfono de ayuda y una web

especializados en menores de edad y en adolescentes todos ellos instrumentos valiosos

insuficientes todos necesitan una validación y una reflexión de carácter anual para proponer nuevas medidas que se vayan adaptando a situaciones

cambiantes y por supuesto en eso tiene un papel muy importante que jugar el profesorado nuestros docentes tienen mucho que decir

que su formación se actualice periódicamente para atender un problema que es muy serio estos son básicamente los ejes sobre los que entendemos que hay que seguir trabajando y que constituyen también el núcleo central que inspira la enmienda de transacción que hemos alcanzado con el grupo elkarrekin podemos al que queremos

que afecta e impacta al menos a mí emocionalmente muchísimo y entendemos que empieza a dar una respuesta adecuada a este grave problema

de que haya habido el clima y el consenso suficiente para atender a un problema que no es de nadie en general que es de todos que es de la sociedad que es de la comunidad educativa

con rigor con generosidad y desde luego con dedicación permanente porque el tema no se acaba con una sola medida necesita mucha tarea también de concienciación social

por parte de todos los colectivos implicados nada más y muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

el señor de las moscas eulien jauna datorkit burura

tuentin zegoen garai hartan tuenti zen es que alguien ha subido a tuenti esta foto

posible izan dela en relación con bizikasi con el informe bizikasi sí que me gustaría un poquito explicar cómo recoge el impacto de la iniciativa en el ámbito

organizativa creada en todos los centros públicos de euskadi profesorado inspección educativa familias y personal no docente que también recoge

y también en personal no docente

un aumento de las posibilidades de intercambio de comunicación e incide claramente en las actitudes y conductas que se dan en el proceso de interrelación añadiendo

en otro término asociado al de la ciberconvivencia que es la ciberconducta y la práctica muestra que este ámbito de la conducta se ha convertido también en objeto de aprendizaje y por tanto tenemos la posibilidad de trabajarlo desde el ámbito educativo

desgraciadamente al igual que ocurre en el ámbito físico las conductas que se dan

interrelación virtual no son siempre positivas ni se desarrollan bajo los parámetros de la convivencia positiva dando lugar a situaciones que vulneran gravemente el bienestar socioemocional del alumnado dentro de estas conductas contrarias a la convivencia positiva pues destaca por su virulencia

un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia por la gravedad de las consecuencias y las dificultades que presenta su prevención y el abordaje se realiza desde un entorno protegido generalmente desde casa desde esa

tener ese móvil en la mano se esconde en el anonimato muchas veces

y no existe ese contacto directo ese cara a cara con la víctima

hacen necesaria la intensificación de las observaciones que se realizan en los centros educativos especialmente en los periodos en los que las relaciones con nuestro

pues no se dan presencialmente en situación de covid no siempre al menos asimismo es fundamental la colaboración con el profesorado sobre todo de los tutores y las tutoras y de las personas que componen ese equipo bat y las familias para orientar

gracias señora presidenta señorías bueno yo también quiero empezar

y agradeciendo al grupo elkarrekin podemos que traiga este debate a esta cámara porque es una de nuestras preocupaciones es una preocupación importante para nosotros y porque entendemos que este efectivamente no debería ser un debate político ni ideológico sino transversal como creo que está

no creo efectivamente que haya nadie en esta cámara en contra de evitar el sufrimiento a los niños y en todo caso nuestras diferencias tendrán que ver más con los detalles o con la forma de hacerlo que con el fondo y nos preocupa mucho el tema del bullying porque sabemos

que hay en este momento muchos niños y niñas viviendo en nuestros colegios un auténtico infierno

pocas causas merecen por lo tanto más la comprensión la atención y el amparo de la sociedad que un niño sufriendo una soledad en soledad de forma tan injusta y cruel como hemos dado aquí ya muchos datos yo no voy a abundar en ellos voy a intentar darles profundidad voy a intentar darles calidad

de una víctima de doce años de una ikastola que decía lo siguiente no sé muy bien por qué ocurrió empezó poco a poco

empujones mensajes sin responder un día en el patio me encontré sola y me puse a mirar el móvil sentada en las escaleras lo que nadie sabía

pero yo disimulaba deseando que fuese la hora de entrar en clase

porque sabía que iba a provocar risas y burlas inmediatas antes de decir nada

lo que no entiendo es por qué el profesor no se daba cuenta y hacía como que no pasaba nada un día cuando subía a clase

me insultaban y despreciaban le ahorro a esta cámara las palabras exactas porque no son admisibles y uno le decía a los demás que había que darme un escarmiento al pasar a su lado se callaron y me miraron de una manera muy rara al llegar a clase me encontré mis libros y mi mochila tirados por el suelo y pisoteados

fea rara y maketa junto a un dibujo de mi cara con granos

yo ya sabía que era por mí no podía entender qué es lo que había hecho mal

cuando entraban los demás en clase y lo leían todos se reían y me miraban

se limitó a borrar la pizarra sin más a mí me estallaba la cabeza

es decir lo que hemos dicho un auténtico infierno vivido en soledad

una edad tan temprana sin saber a quién recurrir y temiendo

como pedir el amparo de sus profesores o ponerlo en conocimiento de sus padres

que en el año dos mil veintiuno se estén produciendo este tipo de situaciones

es ineludible y creo que hay que empezar por clarificar bien las posiciones y transmitir mensajes a la sociedad inequívocos

que entendemos su situación que la condenamos y que haremos todo lo posible por ayudarles

pero también debemos de lanzar un mensaje muy claro para los acosadores y para sus familias puede que estas actitudes les parezcan irrelevantes hemos oído familias que

o incluso que les hagan gracia pero deben ser conscientes de que están incurriendo en delitos graves

y fuese su hijo o su hija el acosado que se replanteen qué parte de responsabilidad tienen en estas conductas y que inmediatamente

para pararlas de raíz entre otras cosas porque son una clara muestra de que la educación que están dando a sus hijos no es la adecuada y con ello están faltando a su responsabilidad de padres y nosotros hoy qué podemos hacer desde aquí desde este parlamento

en primer lugar creo que estamos haciendo lo correcto que es prestar atención al tema

debemos ser muy conscientes de que la causa profunda es compleja pero a veces está en la casa de los niños acosadores allí han podido ver a veces a sus padres justificar la violencia

la intolerancia practicar o justificar conductas despreciativas o excluyentes hacia los diferentes

y a veces se contagian de padres a hijos por tanto la primera actuación debería ir dirigida a realizar campañas sociales de erradicación de las conductas intolerantes irrespetuosas o excluyentes

y sustituirlas por conductas de respeto aceptación flexibilidad cordialidad y acogida campañas dirigidas a los mayores no a los niños

si llegara a su conocimiento lo cual es aterrador en segundo lugar pensamos que la intervención debe centrarse en la escuela los profesores ven todos los días conductas de acoso incipiente

en parte por falta de formación en parte también porque forman parte de la misma sociedad que las genera hay que cambiar todo esto y hacer que cualquier indicio por pequeño que sea

se debe proteger inmediatamente a la víctima interviniendo de forma decidida en el grupo y se debe hablar con los padres de los acosadores en términos muy claros

es verdad que en euskadi tenemos algunas herramientas algunos programas como el programa bizikasi que ya hemos mencionado aquí pero

debemos analizarlo y podemos ver en qué se han traducido realmente estos programas y yo les ofrezco datos y ya ustedes sacan las conclusiones

por qué en el dos mil veinte se acogen al mismo quinientos setenta y tres centros y en el dos mil veintiuno cuatrocientos sesenta y siete ciento seis centros menos por qué en el año dos mil veinte se contemplan seis jornadas educativas para el profesorado dedicadas entre otros temas a este

una es decir seis menos por qué en el presupuesto del dos mil veinte

cero euros por qué por eso les anuncio señores del gobierno que acabamos de registrar cinco solicitudes de información al respecto con la esperanza de encontrar respuesta a algunos de estos interrogantes

como tantos otros lo que hacemos es presentar algo para que no se pueda decir que no hacemos nada para quedar bien pero luego realmente el tema está vacío de contenido y sobre todo vacío de resultados

no obstante nosotros no hemos hecho ninguna enmienda a la propuesta de elkarrekin podemos porque nos parece que estaba bien

y por esta misma razón también les anuncio como ya le anunciamos antes que votaremos positivamente

observaciones a la propuesta repito inicial en su propuesta que yo entiendo que estaba presentada en octubre del año pasado es decir que hace ya unos cuantos meses anuncian que instan al gobierno a incluir en el próximo proyecto de presupuestos tres partidas me refiero a la última parte

el trámite presupuestario del veintiuno y en él no hemos visto ninguna de las enmiendas anunciadas

también tenemos que decir que en el programa cuatro mil doscientos veinticinco sobre innovación educativa y formación permanente del profesorado por la razón que fuese el único grupo que ha presentado enmiendas

por supuesto todas rechazadas por el rodillo gubernamental sin atender a su contenido pero casualmente la primera de las partidas que usted proponía era una partida digo literalmente específica

pues esa es exactamente la enmienda que presentó nuestro grupo señora gonzález qué votaron ustedes

tan poco rigurosa en fin respecto a la enmienda inicial de los grupos que apoyaban al gobierno debemos decir que nos parecía muy conformista y parte de ella se ha recogido en la transacción

que hacer es seguir avanzando seguir reforzando seguir contribuyendo seguir revisando es decir seguir haciendo lo mismo no bajarse del burro y despreciar las ideas que pueda haber al respecto en fin yo creo que ya todos debemos saber que esto efectivamente es una actitud que no debemos de que no es muy aceptable no y en ese sentido me alegro de que la enmienda transaccional la hayan rectificado

eskerrik asko guztioi para mí la verdad es que

quiero agradecerles el reconocimiento a la iniciativa que yo defiendo pero que elaboro con personas

que le pone toda la carne en el asador le pone alma corazón y vida

y que desde luego los tentáculos para que estas iniciativas lleguen aquí vienen de fuera

de organizaciones y vienen de la calle y nosotras somos capaces

con otro lenguaje con otras formas quería decirle a la señora martínez que nos piden sensatez más sensatez y menos ideología yo les pediría a ustedes más sensatez

esos que lanzan contra los menores migrantes contra la diversidad sexual contra las feministas y reivindicar la sensatez por ahí

sé que son difíciles sé que es muy frustrante pero yo les quiero decir que

la escucha tiene una dimensión política que la oposición está aquí haciendo propuestas muchas veces muchas veces sin eco más que lo que llegue más allá de nuestras redes y que es muy importante la escucha y desde los partidos

es muy importante que tengan esa capacidad de escucha y de traducir a veces nuestras peticiones quería decirle al señor gil que bueno presentamos

la empatía hacia quienes sufren el acoso pero bueno que es más importante trabajar a nivel

por el respeto por la promoción de los derechos de la infancia y por darles herramientas que y que no tengan miedo o sea por ahí en presupuestos no se los olvidó

concretamente en esas partidas porque nosotras apostamos por meterlas en las partidas de protección de la infancia es una pena que no esté la consejera artolazabal porque para nosotras tan importante es el peso que tiene este tema a nivel educativo como a nivel de políticas sociales presentamos esta iniciativa con urgencia en su momento

no se consideró con esto quiero decir no quiero decir que no nos importe sino que es verdad que hay en algunos momentos que también se toman

y entonces si hoy décimos que este tema es importante que los derechos de la infancia son importantes que cuando se presenten iniciativas de este tipo también

la importancia necesaria porque sí que debemos considerarlas urgentes todo todo lo que tenga que ver con los derechos de la infancia y siempre siempre tenerlos presente ahora mismo que se está tramitando la ley de juventud o cuando se tramite la reforma de la rgi o cuando se debatan los presupuestos

siempre y que erradiquemos todas las violencias posibles todas las violencias también las que generamos desde las instituciones eh y sigamos en esta línea y no lo olvidemos nunca quiero acabar con el hashtag de ikoitz esan duzu

quiero dejar en el aire unas palabras sensatez escucha empatía generosidad

la aplaudo eso vaya por delante en la transaccional que ustedes han firmado en el punto uno dicen se fomentará el respeto a la pluralidad

y creencia estoy totalmente de acuerdo e insto a que se fomente en el proceso de desarrollo infantil y juvenil para que no se llegue nunca al acoso

y en este parlamento no se está haciendo denuncian ustedes la discriminación del diferente en la escuela y la practican en este parlamento en cuanto se les presenta una oportunidad

esta iniciativa es buena y muy necesaria díganme si no reconocen en este parlamento los siguientes parámetros marginación aislamiento

velar por el mejor desarrollo de niños y jóvenes es velar por el futuro del país vasco y por eso votaré que sí a su iniciativa eskerrik asko martínez andrea

bakarrik pare bat gauza komentatzeko gil jaunari esateko no hay ningún desprecio de ideas

usted lo sabe lo que pasa que hay una cosa que es obvia y es que el departamento de educación y este gobierno vasco fue pionero en este ámbito

pues una carrera de diez años trabajando concretamente en el ámbito del acoso y del ciberacoso en los espacios educativos

que no se puede negar eta arrese

presidenta nada solo un minuto desde el escaño

porque hoy el centro hoy el foco lo deben ocupar las víctimas lo deben ocupar los niños y por tanto

decirles que me ha gustado mucho el debate que me parece que ha habido aportes por parte de todo el mundo y que me parece que

pudiéramos tener más debates de este tipo y lo único que siento o

que esto no sea nada más que el principio de un debate mucho más en profundidad

que dé lugar por lo tanto a un cambio de conductas sociales importantes en ese sentido

con el objetivo de que esto no se quede aquí y que se pueda aterrizar en temas concretos en temas prácticos que hagan cambiar la vida y sobre todo el sufrimiento de los niños que hoy

aipatu da que es importante escuchar es importante pactar pero más importante que pactar me parece

los contenidos que se pacten cuando he dicho que no creo que tengamos que darle carpetazo al tema hoy me refería a que no creo que con seis puntos que pueden ser válidos podían haber sido cuatro podían haber sido doce podían haber sido treinta si todos los grupos hubiéramos metido enmiendas creo que no son suficientes y van a seguir sin ser suficientes para hacerle frente al ciberacoso al bullying y a la vulneración de derechos que sufre

berriz ere gertatzen delako aipatzen direnak direlako seguir avanzando seguir reforzando seguir contribuyendo seguir revisando llevar a cabo

gracias señora presidenta buenos días de nuevo señorías bien seré breve hemos llegado a un acuerdo yo creo que es un acuerdo importante para

economía social en relación con un tiempo también de ahora

nuevas noticias de fomento de impulso de avance de la economía social en el ámbito estratégico en la estrategia española la que sustituye

o el consejo de fomento de economía social que se acaba también de aprobar en cumplimiento de la ley de economía social

hay que seguir trabajando por ahí hay que seguir generando ese impulso ese fomento eso es lo que quiere hacer esta moción esta moción

en la interpelación con la señora mendia con el proceso de elaboración del plan estratégico de economía social

muchas partes del gobierno están llamadas a actuar con la participación del sector importantísimo el sector además es un sector amplio variopinto o sea que tiene muchas cosas que aportar en relación con esta comunicación esta posible comunicación y con este plan estratégico sobre todo para proceder a la remisión a esta cámara se había

el primer semestre del dos mil veintiuno está bien claro que estamos con el tiempo encima será en el segundo semestre de dos mil veintiuno como comunicación del gobierno a la comisión de trabajo y empleo para su debate

para tener un debate monográfico en esta cámara sobre economía social y todo su ámbito de posibilidades y de actuación y aportar los grupos parlamentarios cuestiones porque el tiempo va a decir que la economía social tiene mucho futuro y eso es lo que tenemos que preparar nosotros

en ese ámbito privado que son las empresas de economía social la iniciativa arranca

la disposición está bien claro que esto entronca con una iniciativa con una proposición no de ley

donde la cámara aprobaba que el parlamento instase al gobierno vasco a la elaboración del plan estratégico de la economía social de carácter

interdepartamental implementando los recursos económicos necesarios para su desarrollo todo ello para el impulso de la economía social es decir ya habíamos puesto las bases en ese dos mil diecinueve y esta cámara pedía al gobierno

y ahí hablábamos también de la participación en esa moción en esa aprobación de esa moción de esa enmienda transaccional de todos los agentes de la economía social está bien claro que por ahí estamos

con que esa estrategia que tiene que desarrollar algo

y es bueno contemplarlas porque hay estrategias muy buenas de fomento de la economía social

en ámbitos internacionales tiene que desarrollar algo que tiene un futuro importantísimo la economía social tiene un futuro por su capacidad además de muchas cosas de soportar crisis y por la responsabilidad social que tiene en relación con la participación de los miembros

son miembros empresarios que en algunos casos forman parte de una responsabilidad social desde luego singular y que nosotros debemos

en la interpelación recordábamos que también tenemos

en relación con el fomento de la economía social con su consolidación la ley de cooperativas de euskadi fue aprobada el veinte de diciembre

estratégico de economía social fue un proceso de ampliación están ahora en proceso también esa ley del proceso de ampliación de desarrollo reglamentario bueno estamos en un buen momento para seguir dando pasos en favor de la economía social

el cuatro de junio debatíamos una comunicación del gobierno con una serie de resoluciones muy interesantes y de desarrollo de las políticas de fomento de la economía social en todas sus modalidades

también ha habido nuevas noticias como esa ley de cooperativas el marco internacional el marco europeo la propia crisis que hemos vivido

en relación con el plan estratégico eso está ahí también la legislatura pasada fue importante en algunos aspectos bilbao fue sede de la economía social se realizó el foro global de economía social en octubre de dos mil dieciocho pudimos asistir

de ser impulsada de ser fomentada que es lo que este grupo y esta moción pretendía no sin ir más lejos

instituciones europeas la economía social es la piedra angular de la economía según desde luego algunos de sus importantes documentos

estos debates que ya llevamos impulsando en varias legislaturas

o la más conocida es el cooperativismo pero también son importantísimas y lo han sido otras expresiones de la misma como las sociedades laborales

las asociaciones con actividad económica las mutuas las cofradías de pescadores sociedades agrarias de transformación es decir incluso las cajas de ahorros en su concepción ya algo

en ese sentido como una prioridad porque la prioridad es decir haciendo una buena estrategia en relación con la economía social vamos

completada con recursos completada con esfuerzo económico también de las administraciones una nueva estrategia acertada y efectiva en economía social

básicamente en cosas esenciales y necesarias creación de empleo además empleo de calidad o sea fórmulas de creación de empresas

de economía social de diferentes maneras desarrollo de zonas rurales nuevos nichos de trabajo asociado o sea cuidadores nuevos emprendedores juventud es decir beneficios en empleo y crecimiento económico y social sin duda alguna y además que forma parte de esa iniciativa privada

ingresos para la administración y de responsabilidad social como elementos clave vuelvo a decir y no me quiero extender mucho más hay referencias hay referencias

estrategias de economía social estos últimos años en españa

o sea que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer fortalecer en ese plan estratégico esas líneas de actuación debatirlas también

importante porque impregna también la actividad parlamentaria e impulsa esas labores que tenemos que hacer en el futuro y para finalizar

para avanzar vuelvo a repetir la estrategia que nosotros que este parlamento pidió en su momento que ahora se está trabajando y que se debatirá está perfectamente

y que se debe alinear además con los planes de recuperación económica que existen que están puestos sobre la mesa en muchos ámbitos en este caso también con los planes

tiene que formar parte porque cuando hablamos de las nuevas fórmulas de empleo

de ejemplos claros de las empresas de economía social

plurianuales dos mil veintiuno dos mil veintisiete como todos ustedes conocen

y con el plan de acción europeo de la economía social que se está trabajando desde

de las instituciones comunitarias es decir señorías hay campo de actuación

esta estrategia incardinada es una actuación conjunta que debe ser potente y tener un debate parlamentario con aportaciones porque eso va a llevar al fomento va a llevar al impulso de esa fórmula singular de economía que debe ser desarrollada y que tiene un futuro

la economía social tiene que ser el pilar de la economía ekimen honen jatorrian zegoen interpelazioa ere horren

ekonomia sustatzearena ere aipatzen zuen decía la señora mendia respondiendo al señor barrio en aquella interpelación que tenemos un modelo el modelo de la economía social que es un modelo que sirve de ejemplo en estos tiempos tan difíciles

comprometido con el empleo de calidad con los salarios dignos

sufrimos este es un valor añadido que reconocemos a la economía social y que queremos seguir poniendo en valor

y desde euskal herria bildu consideramos que no podemos perdernos

y la empresa que ofrece la economía social solidaria y transformadora para resolver las necesidades humanas y ofrecer soluciones a los problemas que estamos viviendo

como sociedad porque de todos esos aprendizajes que nos ha dejado la covid

nos ha mostrado la fragilidad de un modelo económico global que prioriza la acumulación privada de riqueza sobre la vida y el planeta y nos ha mostrado la urgencia

de construir un tejido económico al servicio de la sostenibilidad de la vida

que permita el desarrollo de políticas transformadoras

celebramos el consenso alcanzado hoy en este parlamento no sé si hoy vamos a terminar cantando we are the world pero bueno pues es un día de grandes consensos

aunque no se haya alcanzado de una manera muy colaborativa y esto se lo tengo que decir señor barrio gaur zuk ekarritako ekimen honetan euskal herria bilduren

el debate que tenemos hoy es un debate cuyo planteamiento de fondo es compartido por toda la cámara y que se refiere importancia de contar con un plan estratégicode la economía social

y los dos partidos que componemos este gobierno vasco no tuvimos ninguna duda de carácter esencial de la economía social en la estrategia por reactivar euskadi

gobierno y en el propio plan de gobierno existe un mandato parlamentario de la anterior legislatura como se ha dicho para desarrollar la ley que aprobamos el año pasado

se hace tal y como nos adelantó la vicelehendakari idoia mendia este gobierno tiene un doble compromiso en relación al plan estratégico de economía social

y buscando consensos en esta misma cámara y a nosotros nos parece que es como hay que hacerlo y visto el apoyo tan mayoritario que va a tener la enmienda transaccional

de lo cual nos felicitamos en primer lugar de la mano de las cooperativas y sociedades laborales de las cofradías y entidades de previsión social de las sociedades agrarias de transformación y de los centros especiales de empleo e inserción

este es un sector muy amplio y por eso ya en la primera en el gobierno la vicelehendakari idoia mendia se reunió con los que conforman la mayoría de la economía social porque todos son actores imprescindibles en la salida innovadora

a esta crisis y de su mano de lo que se vaya acordando es con lo que se volverá a esta cámara para presentar el plan estratégico de economía social previsto en la ley

y creo que es de justicia reconocer que todos los grupos supieron ver que la economía social es una de las fortalezas de euskadi que el movimiento cooperativo de trabajo asociado es puntero en europa y así queremos que siga siendo pero también es de justicia reconocer que el departamento supo ver una necesidad

para ofrecer una solución una actitud que seguimos reivindicando como la mejor forma de hacer las cosas durante este tiempo de pandemia hemos estado

con tres líneas de apoyo específico a las empresas afectadas por covid pero además de trabajar en lo urgente también hemos continuado trabajando en lo importante como es la elaboración de este plan y tal y como nos indicó la vicelehendakari

para la contratación del servicio de asistencia técnica para la elaboración seguimiento y evaluación del plan estratégico y yo creo que con el doble reconocimiento

y de reconocimiento también de la actitud del conjunto de los grupos de la cámara para apoyar al sector puede entenderse perfectamente la enmienda transaccional a la que hemos llegado y que previsiblemente será apoyada por una amplia

mayoría de esta cámara enmienda en la que instamos al departamento de trabajo y empleo

desde la transversalidad interdepartamental y con la participación del sector porque nosotros también en nuestra enmienda original coincidíamos con la enmienda que ha presentado eh bildu de la importancia de hacer esto de la mano del sector para proceder a su remisión a esta cámara semestre de dos mil veintiuno como comunicación del gobierno a los efectos de que se realice un pleno un debate monográfico en la comisión de trabajo y empleo

con el grupo proponente y yo aprovecho para decir

como si estuviera firmada por todos y cada uno de los grupos que hoy apoyan la enmienda transaccional los socialistas y hacemos nuestras las palabras que dijo la vicelehendakari en relación a que necesitamos un modelo socioeconómico responsable y comprometido con la sociedad con el empleo digno y de calidad y con arraigo territorial a la deslocalización y precisamente ese es el valor añadido del que parte la economía social para la salida de esta crisis en la que estamos

como el que hoy hemos alcanzado y que quiero agradecer al conjunto de los grupos parlamentarios besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

dioen bezala gure ekonomiaren zutabe bat da krisi garai hauetan coincido con usted señor barrio valoro positivamente

como en noviembre pasado valoré también su interpelación es también de nuestro interés seguir impulsando y fomentando la economía social

hoy y en estos tiempos tan especiales como usted decía y también en todo tiempo si nuestro primer objetivo en esta legislatura es la generación de empleo de calidad evidentemente no podemos prescindir de este pilar y hoy debatimos sobre un elemento esencial

si tuviese que titular con una sola palabra la interpelación que usted realizó a la consejera tengo claro cuál sería esa palabra persistencia

no piense usted mal señor barrio no estoy refiriéndome a la acción repetida de una mosca en un día el verano que una y otra vez intenta cosas en el borde de nuestro vaso

como valor valor en la doble aceptación o acepción de su definición mantenerse

de hecho cuando pienso en esa persistencia tampoco estoy pensando solo en usted señor barrio estoy pensando en la interpretación perdón en la interpelación en su conjunto estoy pensando tanto en quien pregunta como en quien responde estoy pensando tanto en usted como en la sailburu

y eso es de destacar yo subrayaría unos hitos de entre esos contenidos en primer lugar las

para no remontarme más allá de tres años atrás efectivamente esas cincuenta y ocho resoluciones en segundo lugar la enmienda transaccional aprobada por unanimidad y relativa al trabajo por un pacto vasco en la economía social del diecisiete octubre del diecinueve

justo reconocerlo de una moción suya y por supuesto la aprobación y como se ha recordado de la ley once barra dos mil diecinueve de cooperativas de euskadi con el importante respaldo de esta cámara como también se ha recordado por todo ello si tuviera dos palabras no una dos palabras para titular esta interpelación esas palabras sería persistencia compartida

utilizadas por la consejera primera idea programa todo este catálogo de contenidos está sintetizado en el programa de gobierno de esta legislatura

un compromiso que está recogido en un lugar principal y a mi juicio estratégico yo entiendo

está o va mucho más allá del evidente reconocimiento que se le da a la economía social de hecho si leemos el compromiso

en ningún momento se habla de reconocimiento que está recogido anteriormente sino se habla de planteamientos de generación de nueva generación

facilitando reforzar su dimensión cuestión importantísima incorporando nuevas personas socias y fomentando el asociacionismo entre ellas

la formación y el fomento del buen gobierno y la responsabilidad social corporativa y como también usted ha recordado incentivando los proyectos de innovación tan necesarios en todos los ámbitos económicos y también en este una segunda idea que también la recogía el señor rico lo urgente y lo importante

la sailburu señor barrio le garantiza en esa sesión

identificando como tal el plan estratégico lo califica ya de importante igual que usted al principio de su intervención

y para mí es fundamental que le da cuenta de todas las concretas acciones realizadas durante dos mil veinte señor barrio usted planteó esta iniciativa en su legítima función de control al gobierno y el gobierno en esa misma sesión le dice que de acuerdo pero que tenga usted en cuenta que ya lo están haciendo

compromiso y fundamentalmente en su segundo turno la consejera le da detalle técnico del estado del plan como aquí también se ha recordado desarrolla los elementos necesarios para tener un plan un buen plan estratégico de economía social

transversalidad del gobierno asistencia técnica método de trabajo participación

con todo el sector y usted sabe señor barrio que el gobierno está en marcha en esta cuestión y yo lo entiendo así porque hace unos días usted

cuando la analizo y tengo que reconocerlo con un poco más de detenimiento del que le presté cuando la registró

el automatismo de su justificación no pasa a mi juicio desapercibido y yo la interpreto

respetuosa con la respuesta que recibió del gobierno dice usted

no por ejemplo un típico una típica justificación así cortita que suele haber de siendo insuficiente la respuesta del gobierno por ejemplo es decir

a mí me pareció un buen inicio su moción tres elementos básicamente ya se ha explicado y no quiero ahondar contenido plan estratégico debate monográfico en comisión tiempo primer semestre del veintiuno nuestra enmienda tiene unas diferencias también se han comentado la referencia al proceso previo de elaboración transversalidad interdepartamental y participación del sector

hacía referencia yo realmente y creo que lo comentamos el señor rico y yo lo dábamos por entendido en su enmienda

una segunda diferencia referida al tiempo y nosotros hablábamos de a la mayor brevedad entendiendo las explicaciones que nos dio la consejera

usted decía hoy mismo estamos ya con el tiempo encima efectivamente ya estamos con el tiempo encima con lo cual pero evidentemente en este momento de análisis

y hoy firmamos un texto que lo ajustamos esencialmente en el concepto tiempo yo creo que hemos todo todos y todas hemos negociado con ánimo de acordar

de todos los grupos parlamentarios firmantes enmendantes y no enmendantes creo que estamos generando esa confianza mutua para afrontar algo

con lo cual nosotros como nuestro grupo parlamentario como grupo parlamentario nos comprometemos a sumar

el trabajo digno y esta estrategia como decía inicialmente es una pieza esencial para ello eskerrik asko eskerrik asko

reiterar lo que todos los que me han precedido la palabra ya

al interés que despierta para la sociedad vasca en su conjunto

es innegable y en este sentido reconocer que la apuesta del señor barrio por insistir en esta materia ya sea vía interpelación así como en la moción y en la legislatura anterior también del mismo modo pues

es de reconocer y también en ese sentido el compromiso por parte de todas las

dar apoyo a la iniciativa hoy no será menos nos encontramos ante una iniciativa que rescata como ya se ha verbalizado

una serie de consensos adoptados ya en la legislatura anterior en relación con el desarrollo

con los agentes implicados así constaba en el acuerdo de la legislatura anterior y en base a un diagnóstico previo del cumplimiento de los acuerdos ya existentes anteriormente en este sentido y siguiendo este hilo

en la legislatura anterior y ahora haremos lo propio

proponente a la hora de exigir la elaboración de dicho plan estratégico que obviamente

a la vista de los compromisos de la legislatura anterior y que este plan estratégico posteriormente se derive vía monográfico en comisión nos parece una vía

a hacerlo en coordinación con los agentes sociales y empresariales del sector cuestión que reflejaba la enmienda de eh bildu y también a su vez la enmienda transaccionada propuesta por parte de los partidos que sostienen al gobierno

los datos están ahí y la economía social aporta mayor estabilidad y garantía en el mantenimiento del empleo que otras fórmulas empresariales no

compañeros míos la pasada legislatura ya expusieron que desde el punto de vista económico y social las principales aportaciones del movimiento cooperativo se condensan en una palabra estabilidad estabilidad en el empleo estabilidad en los salarios y estabilidad en el arraigo de los centros de decisión es decir las condiciones

más protegidos de la incertidumbre y de los vaivenes de esa caprichosa abstracción de los mercados

y lo repetimos hoy la crisis actual ha demostrado que las ideas del dejar hacer de las operaciones especulativas a corto del emprendimiento yupi para vender se ha demostrado ruinosa y la prueba viva de que eso es así

del tejido cooperativo que es más resiliente y además por definición más igualitario el último informe de la economía social publicado por el departamento de la señora mendia refleja perfectamente que las diversas fórmulas empresariales que engloba la economía social tienen mayor capacidad o sensibilidad con la recuperación del empleo el arraigo con el territorio y el compromiso social no es casual por tanto que hasta la actual crisis

dato que contrasta con la recuperación ligeramente por encima del cincuenta por ciento para el conjunto del mercado laboral

sustancial si hablamos de economía social o de otras fórmulas empresariales también resulta

entre las formas de economía social es notablemente superior al de otras figuras jurídicas y es que

representan más de un cuarenta por ciento en el sector

de formas empresariales es decir del abanico de personas que trabajan en la economía social un cuarenta por ciento lo representa en el sector

sin embargo como decíamos y a pesar de esa resiliencia que caracteriza a los agentes de la economía social el mundo cooperativo no es ajeno a las dinámicas de la economía general y en este sentido el desamparo al que está sometido el empleo

hoy pero lamentablemente desde hace más de una década no es ajeno a las cooperativas lejos quedan ya

en el sector industrial alcanzados en las distintas formas de economía social allá

quizás el plan estratégico que hoy reclamamos y que se tiene intención de elaborar por parte del gobierno vasco sea también la oportunidad de impulsar vigorosamente la industria vasca en relación a la economía social

que los acuerdos aprobados y pendientes de cumplir por parte del gobierno vasco

los minutos que nos quedan y tendremos ocasión de hacerlo cuando venga el monográfico

nuestras preocupaciones en relación con ciertas tendencias que se están viviendo en la economía social ya defendimos en la tramitación de la ley de cooperativas

una tendencia creciente a reducir el peso y la representatividad del colectivo societario en favor de un mayor peso del colectivo asalariado tendencia

social a su vez también existe una gran disparidad entre los diferentes agentes bien sean cooperativos

sociedades anónimas laborales fundaciones asociaciones sin ánimo de lucro redes cooperativas

más que desactualizadas se malvendieron y se privatizaron necesitamos evaluar

no solamente el resultado económico que consiguen esas empresas de la economía social sino cuál es su resultado social cuáles son los resultados en materia de empleo pero también de integración de desarrollo

que no todos los agentes que se dicen de la economía social se están comportando como plantea la economía social cuyos objetivos

o transformar el ámbito de lo productivo de la distribución y en fin otra economía posible y en este sentido creemos que hay que atajar la realidad de las falsas cooperativas que es una realidad existente y que en este sentido

en cualquier caso ya digo consideramos que la iniciativa también por su persistencia que se decía aquí

la idea de cumplir aquellos compromisos de la legislatura anterior en relación con

creemos que es la vía adecuada y en ese sentido votaremos favorablemente a la iniciativa planteada eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txandan

señora presidenta y simplemente no para estimular ningún tipo de debate sino todo lo contrario

señor rico al señor aiartza también a la señora kortajarena por su aportación y al señor soto también por su aprobación de la iniciativa y poco

tiene que ser este instrumento pues agradecerles a todos su esfuerzo no hacía una pequeña crítica la señora kortajarena en la relación con lo colaborativo de mi actitud bueno yo he propuesto un instrumento que se trataba de colaborar no usted lo ha aceptado yo creo que hemos trabajado bien en relación con este

los acuerdos o los consensos son posibles cuando debatamos las propuestas de resolución o cuando debatamos

las formas que es el plan el plan estratégico que nos presentará

su expresión en relación con la persistencia y es verdad es verdad yo tengo el honor de haber sido ponente de la ley de cooperativas de mil novecientos noventa y tres y desde entonces he sido persistente en la defensa de la economía social lo he hecho y

o cuando toque en relación con el plan estratégico será el cuarto debate monográfico

el del dos mil once y el del dos mil dieciocho y yo creo que lo que hacíamos es fomentar la economía social

fomento yo creo que desde entonces y desde esos debates se han incluido importantes programas de apoyo en la dirección de economía social de los diferentes departamentos que la han

esa forma de empresa de la que todos nos sentimos orgullosos independientemente de los problemas las empresas de economía social como todas también tienen que estar vigiladas también tienen que estar controladas también tienen que ser fieles a sus principios

como los de la economía social son muy importantes son claves pero

eso es algo que también nosotros desde nuestro ámbito podemos controlar en cualquier caso lo importante es que tengamos ese debate porque

al gobierno vamos a estimular también a las empresas vuelvo a decir que son ejemplo en la crisis económica anterior en esta crisis que estamos padeciendo son ejemplo

y de responsabilidad social muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

en primer lugar para agradecer la actitud de todos los grupos que vuelvo a repetir

si hubiéramos firmado todos los grupos que van a apoyar en esta cámara y me parece importante recordar que va a haber un acuerdo

unánime de esta cámara respecto a esta iniciativa y me parece importante y precisamente también porque cuando hay acuerdos unánimes a mí no me gusta lo de la sobreactuación

porque tendremos oportunidad cuando se dé el pleno monográfico de establecer cuál es la postura de cada uno y de cada una y bueno yo también me uno a la cuestión de la persistencia no sabía yo señor barrio que había sido usted ponente en todas estas ocasiones

de economía social pero le voy a corregir una cosa en esta cuarta ocasión el debate monográfico no será porque usted lo ha propuesto será porque la vicelehendakari idoia mendia

todos sus planes para hacer debate monográfico en esta cámara creo que

efectivamente y vinculado a su comentario referido

le diría dos cuestiones la primera el programa y la ubicación del compromiso sexto dentro de ese programa de gobierno como hemos recordado anteriormente en ese lugar tan

y dentro de ese eje primero del programa de este gobierno y en segundo lugar un elemento que nosotros hemos introducido en nuestra enmienda

pero nosotros recogíamos otro elemento que es la transversalidad interdepartamental

interdepartamental es decir no afecta a un solo departamento sino como antes he recogido afecta a todos

lugar preferente primordial en eje primero y transversalidad además de contar con la participación de todos y ahora como decía el señor barrio

de la globalidad de las fuerzas que estamos en este parlamento para afrontar ese debate monográfico realmente enriquecedor y al agradecimiento que nos enviaba el señor barrio yo solo quiero agradecerle como he hecho inicialmente en mi primera intervención agradecerle su iniciativa eskerrik asko

de mejoras académicas no son sólidos y que lo único que consigue es aumentar el sexismo

eduardo lópez lópez de la universidad complutense de madrid añade que el éxito de la educación segregada si es que lo hay solo ha tenido efecto en circunstancias muy concretas ciertas clases sociales algunas materias y en ciertas épocas

ni para coeducación se financian sus escuelas infantiles los especialistas de apoyo las sustituciones las jubilaciones proyectos de innovación como bikaintasunerantz

en recursos digitales pero no hay ninguna sola partida ninguno de los euros que el gobierno vasco destina a estos centros va a fomentar algo que tenga que ver con la igualdad y decía antes que es cuestión de prioridades es cuestión de elegir en qué se invierte el dinero y este departamento ha elegido

muchas otras cosas para mejorar nuestro sistema educativo y vaya que se puede porque se puede duplicar la laguntza la ayuda udalaguntza que se

se puede multiplicar por cinco la partida que se destina para la limpieza por el covid se podrían por ejemplo y hemos sido partícipes en las visitas que hemos estado haciendo en las últimas semanas se podrían por ejemplo tener veintiséis comedores ecológicos de cercanía y propios como el de gernika solo con la partida que se dedica a estos centros

ha elegido regalar trece millónes de euros a seis centros segregadores y también hay que decirlo que en esta ocasión

amparáis esta decisión porque aquí y sabíamos todos y todas que íbamos a sacar este tema porque a escasos cien kilómetros de aquí en nafarroa

a excepción de la derechona todos los grupos acaban de apoyar exactamente la misma propuesta que euskal herria bildu ha traído a este parlamento eta aukera dugu

bozkatu duzue eta aipagarria da porque la diputada en madrid josune gorospe dijo que el pnv había votado a favor de la lomloe porque traerá mejoras al sistema educativo vasco pero no esperemos a que venga

tomemos propiamente aquí en nuestro parlamento tomemos medidas que la

dice con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva

los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas

eta hemen dago gakoa y no separarán al alumnado por su género es decir repito sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género y tenemos la oportunidad de adelantarnos y de avanzar

algo más paritario adelantarnos a una ley orgánica española una vez más que seguramente en unos meses como he dicho nos imponga esta misma medida pero parece que algunas

ahora por lo menos no queréis y sí se puede hacer porque en cataluña bajo el amparo de la ley de educación catalana ya se les cerró el grifo a once centros que segregaban

el principio de igualdad de mujeres y hombres así como la expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y en el capítulo tercero sobre educación dice

deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función el rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica profesional sesgada no sesgada por el género y me vais a decir que financiar con trece millónes de euros estos centros es fomentar todo lo anteriormente expuesto

hezkuntza segregatzaile hori diru publikoz lagunduko dugun edo ez y me adelanto a los posibles debates que pueda haber al finalizar mi intervención hoy el debate no es si los centros si hay centros perdón que creen que la mejor educación es la que segrega por sexos el debate es si ese tipo de educación la vamos a apoyar con fondos públicos o no eta zoritxarrez askotan eta askok esaten duzuenaren kontra gaur

gracias señora presidenta señorías no es la primera vez que se habla en este parlamento

un debate muy antiguo y muy repetido en muchos países incluso durante los últimos veinte años pero también aquí en este parlamento tiene una larga historia

porque este ha sido más ideológico que pedagógico jurídico y siempre se ha centrado en el tema de si debemos

un cierto modelo o no en buena medida por las connotaciones religiosas o morales que tienen esos centros como hemos visto en la intervención anterior

la concepción de la educación como servicio público ha dificultado desde mi punto de vista un análisis sereno de las ventajas e inconvenientes de la separación de alumnos y alumnas

otra considerar la educación como un servicio público otra el derecho y deber de todos los ciudadanos a una educación básica gratuita

la pretensión de algunos partidos de suprimir la educación concertada diferenciada o no y para poder analizar este asunto con cierta racionalidad y con cierta sensatez voy a analizar en mi intervención tres aspectos distintos separadamente por una parte

por otra parte la posible discriminación en la que puedan incurrir los centros de educación diferenciada y en tercer lugar si se debe o no financiar con fondos públicos a los centros que utilizan este modelo entrando en el primero de los puntos desde el punto de vista pedagógico cuando uno revisa

no hay una conclusión clara al respecto existen partidarios de la educación diferenciada que defienden sus virtudes y detractores que también presentan argumentos sólidos en contra

ya que la psicología diferencial ha confirmado repetidamente que chicos y chicas presentan diferencias significativas

en su forma de aprender en el procesamiento de emociones y en sus motivaciones e intereses

argumentan también el papel de la escuela como espacio de socialización y convivencia en igualdad y alertan del peligro de que una educación diferenciada contribuya a perpetuar estereotipos sexistas que dificulte el empoderamiento de las mujeres y suponga un obstáculo para la libertad de expresión de modelos sexuales no binarios o alternativos verán a mí personalmente la educación diferenciada no es la opción que más me gusta y lo digo con conocimiento de causa

la apuesta de mi partido tampoco es precisamente esta pero creemos que este no es el debate

o la maldad de cada modelo lo que es importante es que se respete la libertad de elección de todos por tanto este debate en realidad va

respecto al punto segundo respecto al efecto discriminatorio de la educación diferenciada tenemos que decir que el tema está ya ampliamente resuelto fue dirimido y sentenciado por el tribunal constitucional en la sentencia veintiuno barra dos mil dieciocho

que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria

y si miramos otros países qué nos encontramos la misma sentencia del tribunal constitucional a la que me refería

y llega a la conclusión general de que el modelo pedagógico consistente en una educación diferenciada por sexos no es considerado internacionalmente un caso de discriminación por razón de sexo según la sentencia

son capaces de efectuar esa interiorización de la igualdad de género en el marco de la educación diferenciada y por ello

a las escuelas privadas en función de su modo distinto de organizar la formación en este aspecto

prevé expresamente en su artículo diecinueve que una distinción en el acceso a la enseñanza por razón de sexo no constituye

son los apropiados fuera del marco de la unión europea

superior de estados unidos se ha basado en la convención de la unesco de mil novecientos ochenta para resolver este asunto

solo aquellos sistemas de educación separada que no proporciona una sustancial igualdad educativa y oportunidades que son dos cosas distintas en los aspectos dice relativos

en consecuencia en estados unidos la educación diferenciada por sexos no es considerada tampoco un caso de discriminación por sexo y acometiendo el tercero de los aspectos habiendo quedado claro que la educación diferenciada no implica discriminación de ningún tipo

que es un tema independiente pues abordemos la cuestión de si existe la obligatoriedad de financiarlo en igualdad de condiciones con los centros mixtos o no y el mismo tribunal constitucional en la misma sentencia a la que me he referido antes dice

en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos dicho acceso vendrá condicionado únicamente por el cumplimiento de los requisitos que se establezca en la legislación al respecto hay que señalar que la financiación pública de los centros educativos privados corresponde a lo establecido

ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca

que señala que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita

que indica que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas

en consecuencia la financiación pública de los centros de educación diferenciada debe regularse con el principio de igualdad sin que se pueda discriminar a estos centros por el modelo pedagógico que utilicen

siempre y cuando cumplan repito los requisitos que marca la ley por supuesto resumiendo

arroja argumentos a favor y argumentos en contra el asunto de la discriminación ha quedado descartado a nivel nacional e internacional y la obligatoriedad jurídica de la financiación pública

no procede y por tanto ya anunciamos que la votaremos negativamente no sin antes señalar en honor a la verdad que está plagada de afirmaciones incorrectas

el origen la fuente de sus datos y de las afirmaciones que ha vertido en la pnl y también la fecha a la que se refieren porque

centros y organizaciones que no les pertenecen se recogen textos tomados de la prensa a la ligera

y además sabemos que la propia asociación a la que se refiere le ha comunicado personalmente estos detalles al autor de la misma sin embargo

nos parece aceptable y en consecuencia la votaremos positivamente

y aunque su fondo lo compartimos consideramos que una enmienda no debería ser la forma de plantear un tema de este tipo y que sería más adecuado que este grupo propusiese este debate con una pnl propia aunque en fin

buenos días a todos señoras señores parlamentarios en primer lugar insisten en llamarlos segregar

no es la segregación es la educación diferenciada tomemos en cuenta este matiz diferenciada porque de hecho hay diferencias entre niños y niñas no pueden ustedes confundir como hacen practicando un triple salto mortal la igualdad en derechos y obligaciones

con la igualdad en el desarrollo cognitivo entre niños y niñas y es que además ignoran sin ningún complejo lo que los psicólogos o biólogos pueden decir al respecto

lo que se pide en resumidas cuentas es dejar de financiar a estos centros cercenar los derechos de los padres a elegir la educación

una vez más su preocupación es la de limitar la de recortar derechos la de que ustedes decidan el qué quién cuándo cómo y dónde educar a nuestros hijos les seré clara nos tendrán enfrente las personas no pertenecen a nadie

conforme a sus principios morales cuál es la propuesta de vox implantar el cheque escolar para que los padres puedan elegir libremente el tipo de colegio al que quieren que vayan sus hijos este cheque además de hacer que los padres se comprometan más con la educación de sus hijos abre la puerta a las familias más humildes

que dada la política actual son inaccesibles para rentas medias o bajas

ese es nuestro lema nuestro principio y nuestro modo de entender entendemos que a muchos de ustedes les parecerá mal que haya colegios que practiquen la educación diferenciada igualmente también les parecerá mal que haya colegios donde se rece por la mañana

quiénes son ustedes para cercenar este derecho de las familias no sé si lo saben pero como bien ha dicho el señor gil hay una sentencia del tribunal constitucional que considera que esta opción pedagógica discriminatoria y es constitucional de hecho es una opción pedagógica más reconocida a nivel internacional con la que cada uno puede o no estar de acuerdo pero en eso consiste la libertad de elección en eso consiste

único y por ello deben seguir siendo apoyadas por fondos públicos muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak pastor jauna

que coincido con el fondo de su propuesta no con algunas de las argumentaciones pero estoy de acuerdo en que determinados centros

y no quieran acogerse a la subvención pública podrán hacerlo también pero en fin el problema es que aquí hemos tenido en españa una sucesión de leyes educativas

una cierta tranquilidad en el desarrollo educativo creo que no ha habido ninguna en todo el desarrollo de la democracia que se haya hecho con un consenso mayoritario o general solamente hubo un momento con la presidencia de rodríguez zapatero y con ángel gabilondo el ministro de educación donde estuvimos a punto

en materia educativa a punto hasta que el pp decidió romper unilateralmente las conversaciones y echó por tierra aquel esfuerzo después sufrimos

que lo que introducía es aspectos claramente regresivos en la educación este último episodio ha sido afortunadamente superado con la aprobación por amplia mayoría de la llamada ley celaá que vuelve

de la defensa de la educación pública con carácter prioritario

la investigación y la apuesta por una educación inclusiva que pone el acento en la coeducación evitando cualquier forma de segregación y esto lo dice la actual ley que es a lo que se refiere la sentencia del tribunal constitucional a la que luego haré referencia porque la tengo aquí y sabía que la iban a sacar ustedes

ni pongamos el foco sobre rechazar o no determinados planteamientos educativos que pueden ser distintos lo que no se puede exigir además de eso es que se les financie permanentemente con dinero público

o segregacionista pues evidentemente a partir de ahora lo podrá hacer pero tendrá que hacerlo con sus propios medios no acogiéndose a la subvención pública

para proteger la educación pública basada en una determinada serie de valores nosotros no somos los que venimos aquí a romper la pana de la noche a la mañana yo coincido con el planteamiento de fondo del señor arrese

inmediatamente se han creado se han sentado las bases para que esto se pueda empezar a corregir y eso es lo que tendremos que hacer a partir de ahora porque lo de la libertad de elección de centros está muy bien bueno pues el que esté dispuesto

del oficial que se lo pague que se lo pague y si no los que se acojan a las subvenciones públicas tendrán que acogerse también a los criterios

no caprichos políticos ni partidarios leyes en este caso las de educación en concreto la ley que se acaba de aprobar establece la apuesta por la coeducación

así lo define la ley en los centros sostenidos con fondos públicos igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados

de que las aportaciones que se les pide son voluntarias y nunca deben condicionar

también establece la revisión de la financiación del sistema educativo ligándola a la función social y educativa realizada efectivamente por los centros educativos

apuesta por reforzar la educación en valores para una convivencia positiva que favorezca la coeducación y la prevención y erradicación

tendrá la garantía de las administraciones públicas al derecho a la educación el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación la libertad de elección de centro por padres madres o tutores legales

a una adecuada y equilibrada distribución entre centros escolares por parte del alumnado por lo tanto se elimina ese concepto de la demanda social

la administración tendrá que velar por una adecuada y equilibrada distribución entre centros escolares y asimismo velarán para evitar la segregación del alumnado

o de otra naturaleza con respecto a los centros privados concertados se señala que corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo del régimen de conciertos educativos a partir de la regulación general establecida por el gobierno el concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico duración

número de unidades concertadas y demás condiciones con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de concierto en ningún caso en cuanto a la admisión de alumnos

sexo religión opinión discapacidad edad enfermedad orientación sexual

y con posterioridad a la tramitación de la ley para abundar más en el concepto

y apoyada por bildu para prohibir en el marco de la ley que la educación concertada no pueda segregar a los alumnos por sexo con el fin de favorecer la igualdad de derecho y oportunidad

los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación por lo tanto es uno de los principios que inspiran la ley fomentar el principio de coeducación en todas las etapas educativas

y a partir de este momento se abre un camino un camino hasta entonces rechazado es verdad en varias ocasiones por el tribunal constitucional

para aquellos centros concertados sostenidos con fondos públicos de hecho andalucía intentó suprimir el régimen de concierto de algunos centros

y el tribunal constitucional tumbó aquella disposición y quedó sin efecto pero el tribunal constitucional es verdad que hace referencia a eso y hace referencia también en aplicación de la ley que en ese momento esté vigente que en este caso es la que es y no la que era

es verdad que este tema hay que hacerlo con prudencia y con mesura para que los pasos dados sean firmes e irreversibles hasta ahora de hecho solo una comunidad autónoma

la extinción de los conciertos estableciendo un año de prórroga para hacerlo efectivo y en euskadi tenemos que empezar a reflexionar también sobre ese camino

concertados que apuesten por la educación e intentando paulatinamente que aquellos otros que mantienen políticas de segregación vayan eliminándola progresivamente

que entendemos que abre el camino para una progresiva eliminación de la situación o bien esos centros

o van eliminando eso que ustedes llaman educación diferenciada y que nosotros llamamos segregación por sexo porque es lo que aplican sé que hay distintos pedagogos con distintos criterios pero oiga usted si usted quiere acogerse a un modelo educativo que no está amparado por la legislación vigente

lo que no puede pretender es cuando se habla de la libertad de elección es que además se le pague lo que usted

y la educación pública como todo estado de derecho opta por un determinado modelo y todos los modelos que inspiran la europa occidental se inspiran en el criterio de coeducación

incluidos aquellos centros privados concertados que por cierto son muy pocos por ejemplo en comparación con el país vasco donde es verdad que tenemos una cierta anomalía porque la mitad de la red educativa es concertada y la otra mitad pública cosa que no ocurre en ningún país del mundo y tampoco en el resto de españa por eso nosotros defendemos esta enmienda

el representante de bildu entendemos que los pasos hay que darlos poco a poco progresivamente y asentando en el tiempo las reformas que se ponen en marcha

los pasos dados con mesura y asegurando el trayecto que se hace suelen acabar bien y esa es la apuesta que hace esta enmienda que presentamos con el partido nacionalista vasco que en el fondo coincide con lo que plantea el señor arrese

que no coincide en absoluto con su planteamiento pero en fin eso no es nada nuevo ya sabemos que la derecha tiene otra concepción distinta de la educación

de los centros públicos de la comunidad autónoma es el contemplado en el artículo ochenta y cuatro de la ley y el artículo tres del decreto uno barra dos mil dieciocho de nueve de enero sobre admisión

como a los concertados reproduce el texto que se ha modificado para el apartado tres del artículo ochenta y cuatro de la ley anterior

en el procedimiento de admisión eta guk uste dugu hor oinarria dagoela

no me gustaría que este debate se centrara en un tira y afloja de artículos de modificaciones de decretos y sentencias judiciales que además el señor gil ha explicado muy bien pero creemos que son importantes son importantes porque son la base

deben de trabajar los diferentes gobiernos con responsabilidad en materia educativa y efectivamente ha habido pronunciamientos tanto del tribunal supremo

las últimas resoluciones en el sentido de que la educación diferenciada por sexos no constituye por sí misma discriminación por razón

por tanto la mera redacción de ese artículo ochenta y cuatro punto tres

aprobada que es coincidente además con nuestro decreto con el artículo tres de nuestro decreto doscientos noventa y tres barra mil novecientos ochenta y siete no se extrae

en definitiva para prohibir el concierto con los centros de educación diferenciada por sexos no es suficiente la referencia al artículo ochenta y cuatro punto tres

una disposición normativa que expresamente obligue a los centros a no excluir la admisión en función del género eta hau ez da eman espainiako kongresuak ez du

dagoeneko errealitate orokortua baita euskadin la ley de la escuela pública vasca definió la escuela pública como plural bilingüe democrática al servicio de la sociedad vasca enraizada social y culturalmente en su entorno

compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad al tiempo que señalaba como uno de sus fines asegurar el carácter coeducador de la enseñanza que se impartía y más allá de la escuela pública este criterio de coeducación ha sido perseguido desde hace décadas también

en euskadi siguen existiendo muy pocas instituciones educativas que apuesten por la aplicación de sistemas de educación diferenciada la ley para la igualdad

dice textualmente para el sistema educativo vasco que las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo el rechazo de toda forma de discriminación

ez por estas razones y por otras no presentamos enmiendas y apoyamos esta iniciativa es una iniciativa de sí o de no

de la democracia en la escuela de la defensa de la igualdad se respalda y es lo que nosotros haremos es una iniciativa que nos gustaría

no por la iniciativa si no por el problema que trata gracias a la labor de este grupo y también de otros grupos

se ha venido denunciando en los últimos años que más de trece millónes de euros anuales de todos

que viven y pagan sus impuestos en euskadi han financiado este tipo de colegios colegios segregadores pero además en nuestro caso en euskadi elitistas y vinculados o al opus dei o a la patronal

dispositivos digitales planes de apoyo educativos programas de excelencia y escuelas infantiles y estoy en desacuerdo con una cosa que ha dicho

que no hemos invertido en programas de igualdad en estos colegios si después de leer las cosas que voy a leer después todavía pensamos que es posible hacer algo pedagógicamente en materia de igualdad en esos centros mientras sabemos en este parlamento vienen

a reivindicar una educación pública de calidad con infraestructuras dignas o más personal por ejemplo en la pasada legislatura la patronal de estos centros coas tuvo la gentileza de enviarme una carta

explicando lo que para ellos es la educación diferenciada no había argumentos pedagógicos no había argumentos científicos y no había argumentos totalmente morales que para mí están totalmente fuera de este debate otra cosa es la ética

para muchos chicos los deportes de contacto físico pueden no solo ser divertidos sino que de hecho ponen la base para una duradera amistad

en los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan esto es lo que dice la patronal es decir quien imparte la educación en estos centros

hace deporte de contacto y tiene unas amigas estupendas

dicen también es mucho más fácil explicar a un grupo homogéneo y diferenciado el niño además el niño se siente mucho más tranquilo que en clases mixtas

de gustar al de al lado que de atender lo que les dice el profesor

perlas del mismo signo no sé en qué siglo vive esta tendrán el reloj en dos mil veintiuno pero la ideología la tienen

hace bastante tiempo o qué tipo de perversiones les pasan por la cabeza para poder decir escribir editar diseñar y enviar a esta casa y a otras casas este tipo de publicaciones frente a estas creencias y esta moralidad o falsa o una dudosa moralidad la ciencia a través de un artículo que ya ha sido citado

y hay muchos más ejemplos la pseudociencia de la escolarización por sexos dice

el mismo estudio dice que la separación por sexos equivale a segregar

o procedencia y no hace más que aumentar los perjuicios existentes y la inequidad

colegios que segregan por origen o por raza también en nuestra comunidad

con tal cantidad de dinero ni siquiera con un solo euro a los centros segregadores elitistas que tenemos en euskadi de la enmienda del partido popular ciudadanos no voy a comentar mucho porque después además después de escuchar también la argumentación pues bueno somos mundos alejados que en este tema creo que no nos vamos a poder poner de acuerdo pero sí que la enmienda del partido nacionalista vasco y del pse pues bueno sí que me ha sorprendido

hacer alguna pregunta oral en comisión o en el pleno no sé si se mantiene la misma opinión por parte del gobierno vasco que decía la

este modelo educativo no es discriminatorio y lo digo por la enmienda porque hablan de cumplir la normativa pero el señor pastor sí que ha hecho referencia a

arrizabalaga bajaba un poco el suflé de la lomloe

de esa ley pero la ley es clara y dice lo que dice y se desarrollará y si no es con esta iniciativa de bildu pues en unos meses va a estar pero parece ser que no hay

a estos centros la lomloe la aprobamos cuatro grupos de esta cámara esa enmienda

el señor pastor y con el apoyo de bildu está perfectamente en vigor es que en su punto dos hablan de priorizar los centros concertados coeducativos bien estamos de acuerdo pero cómo casa con seguir financiando la segregación por sexo que ya no es los argumentos que decía el señor gil de estados unidos no los he leído lo que piensa y lo que son los argumentos pedagógicos de la patronal

cámara seguramente a disposición de todos

coherente y en el punto tres se dice

y la ley de igualdad claramente la ha explicado el señor arrese ha citado el artículo

la subvención de políticas que discriminen por tanto no parece tampoco muy coherente mantener las subvenciones a políticas que discriminen con la ley de igualdad no hay excusas por tanto para ir acabando me gustaría citar a marina

barcelona y dice lo siguiente educar separadamente solo tiene sentido si se parte de la idea de que de cada sexo ha de tener una distinta función social

y sigue diciendo una educación separada lo que hace es fomentar los viejos estereotipos de la división sexual tradicional que hoy no tienen sentido en nuestra sociedad para elkarrekin podemos e izquierda unida lo único realmente importante no estamos hablando ni el grupo proponente ni nosotros lo estamos haciendo ahora mismo del modelo concertado o público que saben cuál es nuestra postura estamos hablando de los colegios que segregan que en euskadi tienen encima el agravante de que son colegios puramente elitistas para ricos y para ricas lo que realmente nos importa a elkarrekin podemos e izquierda unida es la educación

radical entre seres humanos algo lógicamente difícil de conseguir

y laica basada en la coeducación es imposible mantener ni un segundo más los argumentos para financiar estos centros porque

pero tendrá opinión política para ello o podrá el gobierno vasco decir bueno

y voy a dejar de financiar a estos centros pero no se hace lo ha dicho el señor pastor pero luego en la enmienda

no pensamos que hay otra opción de voto en esta iniciativa que no sea el sí eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

y yo hoy me voy a acostar sabiendo que en este parlamento hacemos debates ideológicos y hacemos política bien dicho esto quiero reafirmar el debate de hoy el debate que hoy traemos aquí no es

estos seis centros a los que he citado anteriormente el debate es si vamos a seguir financiándolos con dinero público o no tendríamos argumentaciones todas y más

pero hoy no nos metemos en eso hoy el tema a debate es si vamos a seguir financiándolos con dinero público o no pastor jauna

legebiltzarkideak esaten didazue poco a poco

guzti hauetan y voy a decir también que me parece una pena y me parece sorprendente que no hayamos podido llegar a ningún tipo de acuerdo porque yo sí estoy de acuerdo

algunos de sus portavoces en diferentes espacios la ministra celaá ley que también tuvo el aval o el pase de euskal herria bildu

que separar por sexos en la escuela es una involución un retroceso y un anacronismo unas declaraciones ideológicas y políticas de la ministra celaá que también hago mías pero el consejero bildarratz

esan zuen preguntado si el gobierno vasco dejará de subvencionar a través de los conciertos a los centros de diferencian por sexos tal y como recoge la ley celaá

la norma cuando entre en vigor porque es una ley básica

neurria bera aplikatzeko pero es que también tengo unas declaraciones

del pnv a quien preguntando por la educación concertada

dice otra cosa es a los colegios que segregan por sexos pero tenemos que ir avanzando nos parece bien que las familias tengan

principios generales que se deben atender si se quiere recibir dinero público y hoy en día dice andoni ortuzar no lo dice ikoitz arrese hoy en día estamos haciendo un esfuerzo enorme

por la sensibilización que a una edad tan temprana

y lo paguemos con dinero público pues no me parece bien a mí tampoco eta aurkeztu duzuen

el régimen de conciertos educativos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación guk inongo momentutan ez dugu horren inguruko aipamenik egin eta

muchas gracias yo creo que a este debate le va bien el análisis

discriminación de conceptos a pesar de que a veces nos empeñamos en confundirlos por ejemplo estamos sistemáticamente mezclando educación diferenciada con discriminación

es que no tiene nada que ver una cosa con la otra es que hay centros

que hacen discriminación porque la educación mixta no es antidiscriminación

y podemos tener por lo tanto también centros de educación diferenciada que no discriminen por lo tanto por favor no mezclemos las cosas porque son cosas completamente distintas

señor pastor yo entiendo de su intervención que el cuerpo le pide es votar la propuesta de bildu

en fin eso explica muchas cosas en todo caso estamos de acuerdo

estamos de acuerdo con esto no y también en que los centros que no cumplan la ley no deberían de recibir subvención pública los que no cumplan la ley pero por lo demás

de frases o de textos que efectivamente son creencias y claro si nos metemos en el terreno de las creencias pues en fin aquí florece toda una cantidad de variedades

pero qué vamos desde aquí a decir qué creencias son las buenas y cuáles son las malas a imponer las nuestras

que nos parezcan aceptables porque y además aceptables a quién y con qué criterio mire repito este es un debate

y aunque haya creencias que no me gustan o que no le gustan a usted tenemos que respetarlas y tenemos que dar opción a que la gente pueda elegir claro cuando el señor pastor dice que se lo paguen con su dinero lo que está diciendo en realidad es libertad solo para los ricos

los demás los demás tendrán que pasar por la educación que él quiera o que alguien quiera por un modelo concreto por unas creencias concretas y por unas concretas

muy socialista es decir solamente libertad para los ricos

los pobres tienen que ir a donde no les quede más remedio no a donde queramos a donde les impongamos en fin repito

y ahí nos van a encontrar siempre y también en que debe cumplirse la ley para que se

respeto a la libertad que creo que es lo que realmente importa gracias eskerrik asko gil jauna

pero ahora viene a decirnos incumpla usted la ley y haga lo que nosotros decidamos que hay que hacer ya sabemos que ese discurso

ustedes son partícipes de la ley de educación que está a punto de entrar plenamente en vigor

haga lo que nos parezca conveniente aquí sin tener en cuenta la legislación general nosotros no jugamos a ese juego ustedes ya sé que por lo menos amagan con hacerlo de vez en cuando no por lo tanto

la ley dice lo que dice la disposición adicional lo concreta todavía más por lo tanto ahí se abre el marco normativo necesario

lo regule y eso es lo que viene a decir la enmienda que hemos firmado con el partido nacionalista vasco en fin el discurso que me hace el señor gil pues en fin señor gil es el del partido popular de toda la vida

usted será de ciudadanos pero lo que le sale por la boca es pp hasta sus últimos extremos

pero una sociedad democrática que se organiza a través de partidos políticos que aprueban leyes y las leyes marcan un escenario general en el que todos nos acogemos si queremos salirnos de ese marco porque nos gusta otra cosa distinta entonces nos la pagamos de nuestro bolsillo y no no solo es para ricos es todo lo contrario

todos los ciudadanos españoles tengan el mismo derecho que los que tienen más dinero o los que tienen poco para poder elegir una educación que sirva

o los caprichos que algunos quieran tener se los tendrán que sufragar pero eso es algo que no me lo estoy inventando yo en españa así funciona en francia en alemania en bélgica

que se pasean por europa tomen ejemplo también de unas cosas y no solo de las que les interesan en esos países la prioridad es la educación pública

que quiera elegir su propio modelo educativo acertado o desacertado el que les gusta pero se lo pagan aquí no

determinados criterios pedagógicos que tiene una parte de la población y que se lo sufraguemos a escote

un régimen democrático ni eso es un estado

a ver si va a resultar que ahora los de la minoría tienen que tener preferencia en un estado de derecho parece que no

si ustedes lo ven así pues no me extraña que tengan los apoyos que tienen

zure lomloen agertzen da bai y la lomloe el pnv el partido nacionalista vasco votó en el congreso de los diputados no es nuestra ley no por definición todas las leyes de educación aprobadas en madrid

importante es que nuestro sistema tenga encaje en ellas

complicada de posibles judicializaciones que parece ser que es lo que quiere en este caso el grupo proponente el partido nacionalista vasco intentó en el congreso de los diputados matizar y presentar enmiendas

de las comunidades autónomas yo no sé lo que andaría el partido socialista pero el partido nacionalista vasco andaba en esto mirando aquí mirando a euskadi y mirando a nuestras

el objetivo del partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados y creemos que lo ha conseguido porque nuestro modelo educativo tiene encaje en esa ley y sobre todo lo que era más importante para todos nosotros y nosotras era derogar

que aquí una y otra vez durante las pasadas legislaturas euskal herria bildu había pedido derogar había pedido derogar y luego cuando llega la hora de la verdad y toca decir

esto no es yo a ti te digo sí pero a ti te digo no esto es una ley se quita con la otra qué es lo que dijo

eskumako gauza dela eta herrialde ugaritan ezarritako zerbait da ezkerra zein eskuma esto no es una cuestión de derechona rancia en europa en alemania en francia reino unido canadá

esto no es una cuestión de derechona rancia esto es esto es esto

la educación segregadora y en particular aquí en euskadi es discriminatoria sí es una opinión

en la anterior intervención qué la educación mixta tiene problemas y ventajas y en euskadi el sistema educativo creo que desde la oposición tenemos el deber también de impulsar iniciativas para el gobierno vasco que mejoren los problemas y hay una cosa en la que por mucho que votemos en contra de la iniciativa de pnv pse que estamos de acuerdo en la parte de la coeducación etcétera bueno pues reforcemos eso pero no mezclemos

con la otra estoy de acuerdo señor gil hay que estar acuerdo en la no discriminación pero es que la no discriminación está presente todos los días y a través de la ideología

de la patronal de los centros concertados respeto absoluto de hecho creo que las personas que

lo único que estamos diciendo es que desde el erario público no debemos de financiar las creencias particulares

de nadie y que se debe de respetar y defender con toda la intensidad del mundo el derecho a desarrollarlas en el ámbito

pública la educación pública y la concertada se basan en proyectos pedagógicos que tienen además que están

vigente no son creencias no son creencias son proyectos pedagógicos y son leyes no es lo mismo y nosotros lo que defendemos son las leyes educativas y ahí defendemos también nuestras posturas acerca de las mismas

libertad libertad sin igualdad

pudiente para que haya libertad tiene que haber igualdad sin igualdad posible y ahora mismo no pueden mezclar esos dos argumentos hablar el último tiene ventajas y tiene desventajas ahora mismo puedo hacer preguntas pero nadie me va a responder pero seguiremos hablando de ello señora arrizabalaga decía

adierazpen bat el parlamento vasco declara eso es lo que decía el primer punto de la iniciativa del señor

parlamento vasco para eso estamos en un sistema democrático un sistema parlamentario puede hacer una declaración política no vale estamos de acuerdo entonces lo que ustedes no han querido

inicial es todas y cada una de las palabras que ha dicho el señor pastor excepto los plazos que es lo que dice la primera parte de la iniciativa del señor arrese

el partido socialista eh bildu y nuestro grupo estamos de acuerdo

en esa primera descripción porque de hecho las palabras del señor pastor han sido

no creo que las mías hayan sido muy gruesas pero han sido incluso un poquito más elevadas que las mías

a respaldar ustedes no y el pnv yo estoy seguro que no hay

esté de acuerdo incluso con ese primer punto por mucho que la ley no lo diga es una declaración política del parlamento vasco y tenemos

para hacerla porque encima no tiene ninguna consecuencia jurídica y no vamos a hacer un debate sobre ese tema pero el parlamento vasco tiene esa declaración política señor erkoreka no tendría ninguna consecuencia jurídica la segunda parte sí la segunda parte la de dejar sin financiación que si les he dejado a huevo si no había plazos si se podía negociar

algo hay detrás que no nos han querido contar en el día de hoy y yo no he hablado de

coherencia con postulados pedagógicos que se defienden desde el departamento de educación con la mayoría además estamos de acuerdo

somos capaces de que este parlamento se ponga de acuerdo haga una declaración política en torno a este tema que es un tema además tan minoritario

pues no sé muy bien para qué hemos tenido este debate eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu